gracias señora presidenta buenos días lehendakari consejeros señorías como pueden imaginarse estos no son unos presupuestos que representen lo que en vox defendemos no son unos presupuestos que busquen la defensa de nuestra cultura nuestras tradiciones y nuestra identidad nacional estas cuentas pretenden justo lo contrario más privilegios

más distancia nula cooperación con las comunidades vecinas salvo aquella que se pretende anexionar y también nula solidaridad con españoles nacidos fuera del país vasco en cuanto a por qué no hemos presentado enmiendas parciales a estos presupuestos quiero recordarles como anécdota

que no merecieron la más mínima atención por parte de ninguno de ustedes la razón el perverso juego que practican los partidos del cordón antidemocrático

a eliminar empeñados en señalar a vox como un partido

todo vale contra vox y después pasan cosas en la calle hay violencia de odio dirigida contra todo aquel que se signifique con vox cordón al que por cierto

al inicio de la tramitación parlamentaria de estos presupuestos pero no se equivoquen

no es la causa por la que no presentemos enmiendas parciales

supone estar parcialmente de acuerdo con estos presupuestos y nada más lejos de la realidad en vox rechazamos de pleno la totalidad de estas cuentas

en un gasto político escandaloso innecesario y duplicado con respecto a la administración central y contaminados íntegramente por la agenda dos mil treinta

el objetivo de estos presupuestos no son las personas menos aún sus intereses satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas no

es la superación de un estatus político profundamente insolidario es consolidarse en el poder a base de estómagos agradecidos y de convertir en ciertas realidades que no lo son pero en este breve período de tiempo que tengo de exposición un tercio del de cualquier otro grupo gracias al cordón antidemocrático que nos han impuesto

sí voy a facilitar algunas cifras tan elevadas que justifican la no presentación de enmiendas parciales y solamente la de totalidad pues nuestra distancia con estos presupuestos

y empiezo no nos cansamos de denunciar la línea editorial de e i te be el inmenso gasto al que obliga el mantenimiento de un ente fundamentalmente parcial que pagamos todos pero que solo sirve a los intereses de alguno pero la realidad es que es un flagrante despilfarro destinar ciento sesenta y uno millónes de euros

que hace de esa diferencia seña de identidad que construye su euskal herria a base de información sesgada de línea política secesionista

otro elemento para la secesión es su política lingüística desde la restauración de la democracia el euskera ha sido un elemento diferenciador una seña de identidad del buen vasco y no hay mejor vasco que el que no quiere saber nada de españa podría centrarme también en esos muchos millónes de euros que ustedes destinan a la euskaldunización de adultos que además ya deberían de haber sido euskaldunizados de acuerdo con la imposición de su política lingüística en la educación

millónes de euros que se malgastan en la consolidación de una de las lenguas oficiales por encima de la otra y qué decir de parís de nuevo sucedáneo de embajada vasca en francia funciones difíciles de imaginar uno coma uno millónes de euros de un total de once millónes destinados a la acción exterior vasca

o esos cincuenta millónes presupuestados para cooperación al desarrollo dinero que no contribuye a resolver dramas de país y que en muchos casos son generadores de procesos migratorios

todo aquella cooperación para concentrarla donde mayor impacto vaya a tener allí donde las necesidades sean mayores y dirigidas al interés general de españa

institutos con funciones y objetivos borrosos duplicados con un plantel de directores cargos intermedios y trabajadores que viven de hacer entre poco y nada

por su parte como ustedes bien saben vox no comparte su diagnóstico de género

homogéneo la mujer sistemáticamente amenazada discriminada y violentada por otro colectivo homogéneo el del hombre veo diferentes manifestaciones de violencia en y fuera del entorno familiar algo que en estos presupuestos no se materializa por ningún lado

en la colectivización de la mujer y que nos traten como débiles como indefensas que sin papá estado estaríamos al albur de los violentos creo en las mujeres fuertes que prosperamos por nosotras mismas y sacamos adelante a nuestras familias con nuestro esfuerzo y sacrificio

yo ocupo este lugar privilegiado junto a ustedes también gracias a mi esfuerzo y mi determinación no gracias a ninguna cuota o favor que ustedes me conceden es más resulta escandalosa la cifra que da el propio gobierno vasco

del total y no me lleven al terreno del conmigo o contra mí si fueran dos mil millónes para luchar contra la violencia intrafamiliar mi opinión sería otra

obviando el resto de las violencias que no gozan ni merecen su protección en esta línea emakunde es un ejemplo de despilfarro ideológico globalista siete coma tres millónes de euros para la mujer

no a quienes de verdad necesitan una atención concreta específica urgente siete coma tres millónes de euros para evaluar políticas propaganda acciones con perspectiva de género para la discriminación de un sexo sobre el otro

que prioriza un falso cambio climático sobre el pan que nuestros trabajadores llevan todos los días a su casa y más gasto superfluo españa ya tiene su defensor del pueblo el del pueblo español

por los tribunales sobre la presencia del castellano en la escuela catalana pero el defensor vasco tampoco hace mucho más ararteko que tiene un hermano mayor en el ámbito nacional concentra algo más de seis millónes de euros invertidos en gasto de personal un coche nuevo y poco más

es gasto de marcado carácter ideológico absolutamente prescindible y en la experiencia además está la prueba

este gobierno insiste en gastar cada año más de siete millónes de euros la defensa del euskera que todo lo contamina y que en este caso sirve para condicionar la línea editorial de medios de comunicación para garantizar un presente solvente a los más afines al nacionalismo y al secesionismo

y también del resto de españa gogora es el instituto de la desmemoria

por la reconstrucción de la historia reviviendo lo sucedido hace ochenta años foco principal de su trabajo y relegando a un segundo o quinto puesto a nuestro pasado más reciente

cuya extensión es también palpable en este parlamento casi cinco millónes de euros de inversión en desmemoria para preparar el terreno para alianzas antes impensables con quienes siguen sin pagar peaje alguno por su complicidad con eta con quienes agasajan al etarra mikel antza cuando va a declarar por su implicación en el asesinato de gregorio ordóñez

condenado a más de dos mil años de prisión por veintidós

con estos pactan ustedes señorías solo el apoyo de eh bildu a estas cuentas aunque sea en forma de abstención es razón de peso para rechazarlas por vox

jamás nosotros trabajamos por la reconstrucción nacional por recuperar la unidad

nada que ver con su construcción nacional vasca nuestra alternativa no son parches a sus cuentas a las que hoy van a ser aprobadas nuestro proyecto se llama más agenda españa alternativa racional a las agendas globalista

además de impuestas muchas gracias eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen

miembros del gobierno señorías a nuestro grupo le hubiera gustado mucho observar en estos presupuestos que deberían ser los presupuestos de la recuperación un avance desde un triple punto de vista el jurídico

y el político pero desgraciadamente nos hemos encontrado con unos presupuestos que siguen la línea de los anteriores y que por consiguiente repiten sus errores y deficiencias

en el corto plazo en el futuro a medio plazo y sobre todo a lo largo de las próximas generaciones miren señorías

les planteamos una

una enmienda a los ingresos precisamente nosotros planteamos

sus partidas presupuestarias y dado que tenemos una cantidad importante

que tampoco estarán generando ningún interés a diferencia de la deuda que sí que nos está generando un interés nosotros planteamos unas alternativas devolver ese dinero al sector productivo a los ciudadanos ya que el gobierno era incapaz de gastarlo y además

de un proceso que durase incluso el resto de la legislatura nos encontramos con el portazo del gobierno yo creo que aquí el gobierno estaba más preocupado de que pareciera a ver quién se levantaba primero de una mesa en la que nunca realmente se nos invitó parece ser de buena fe

hice yo alguna gestión para tener una reunión con el señor consejero y plantear de verdad unos presupuestos desde el principio no unos presupuestos en los que

a cambio a lo mejor de un mínimo o de un par de cláusulas más cosméticas

que haya unos presupuestos para la recuperación de la economía y del empleo bien no se nos escuchó

pero esos retos siguen ahí los retos son por todos conocidos tenemos un reto importantísimo el envejecimiento de la población

la huida de los jóvenes a otras comunidades por cierto que ofrecen oportunidades

pues mucho más abiertas y parece ser que más atractivas que las nuestras

el sector productivo está en una situación muy complicada los datos del paro que son a los que siempre se aferra el gobierno vasco para intentar vendernos que ahora mismo euskadi es distinta

están excluidas las personas que están en este momento disfrutando o en este caso obtienen la prestación de los erte bueno pues tampoco hemos encontrado ahí digamos

no obstante presentamos una serie de enmiendas no presentamos treinta ni presentamos doscientos ni trescientos le presentamos hasta mil quinientos enmiendas

de mil quinientos enmiendas que hemos presentado ni una sola enmienda ha sido buena para los grupos

es esta nueva mayoría junto con el grupo eh bildu esa ha sido la tramitación de los presupuestos hasta este momento en la que lógicamente ya se sabía que los presupuestos estaban aprobados por contar con la mayoría de los partidos que sustentan al gobierno pero además a la que

se ha adherido también el grupo parlamentario eh bildu nosotros no podíamos hacer algo parecido porque estos presupuestos no representan lo que necesita el país vasco en este momento desde el punto de vista jurídico y por imperativo no solo del artículo ciento treinta y cuatro de la constitución o del cuarenta y cuatro del estatuto de autonomía sino de la normativa presupuestaria por cierto normativa presupuestaria que todas las leyes de presupuestos acaban excepcionando en la práctica en el país vasco pero bueno

el presupuesto no deja de ser un mandato dirigido al gobierno un mandato dirigido al gobierno para que este no se extralimite en el gasto ni destine los recursos

a los previstos por la ley por ello nos parece un grave retroceso en las prácticas democráticas que en esta ley siguiendo también lo que ha sucedido

se incluyan tantas excepciones a lo que es la aplicación del decreto legislativo uno barra dos mil once sobre las transferencias de crédito

supone que hoy dadas las mayorías que se han configurado cuando se apruebe

para que luego realice una serie de ajustes sobre la marcha sin el control parlamentario

ya no la caja con el dinero sino la caja y la llave

a veces vienen cosas que no hemos visto aunque hay algún parlamentario que insista en advertirle al consejero de economía mediante cientos de preguntas pero bueno aun así yo puedo entender que oiga pues se le ha pasado

pero en fin yo puedo entender en ese caso que haya que hacer algún tipo de ajuste sobre la marcha también puedo entender

pues los fondos europeos que nos puedan corresponder pero eso es una cosa

afín en este momento al gobierno actual sino porque esto supone un retroceso en lo que es la práctica democrática y sobre todo la práctica de control por parte de este parlamento además por cierto se ha aprovechado

ya estamos copiando aquí se decía que no utilizábamos o que no copiábamos las técnicas o las malas costumbres del congreso de los diputados

a las entidades locales al país vasco en los términos que diga la propia ley vasca que eso ya

esa enmienda en el proceso legislativo propio que era el de la ley del tribunal de cuentas pero bueno

la ley desde el punto de vista económico señorías en tercer lugar podemos afirmar que estos presupuestos

el llamado cuadro macroeconómico los indicadores fundamentales de crecimiento de empleo de situación y de coyuntura

ni tampoco son adecuados para enfrentarnos insisto de nuevo a los retos que esta sociedad

próximamente y sobre todo el fortalecimiento de nuestra economía y la recuperación del empleo que nos pille con los deberes hechos es muy necesario el señor consejero lo sabe no lo suele

que se está gestando una tormenta cada vez más perfecta cada vez más complicada va a ser luego de gestionar

que de verdad transforme la economía y que de verdad implique que cuando llegue esta crisis el sector productivo se encuentre con las armas necesarias y en una situación adecuada o bien se puede hacer lo que se ha hecho que es mirar para otro lado

con lo que se suele hacer habitualmente no son presupuestos para corregir los problemas habituales tampoco como a los que aludiré a continuación sino que inciden sobre los mismos defectos que los anteriores y al incidir sobre los mismos defectos que los anteriores van a acabar dificultando aún más la salida de esta situación

brevemente en algunas cuestiones que he comentado miren lo del cuadro macroeconómico nos es que yo tenga una obsesión con que cada mes a ver

en ese mes sacar el dato del crecimiento o el gobierno vasco que lo hace cada trimestre etcétera pero es que se le viene diciendo a este gobierno a lo largo de todo este año pasado

yo creo que un poco fantasiosas es que cada vez que el gobierno vasco establece una previsión de crecimiento ya le advertimos que es que todos los indicadores principales

que hombre se está pasando un poco por lo menos dos tres puntos en algunos casos y

ya no hablo de las últimas correcciones que le han hecho unas instituciones el fmi antes de ayer para españa es que

la nota de prensa que acaba de sacar hace relativamente poco ya nos ha dicho que es que crecemos menos que españa un uno coma seis por ciento menos que el resto de españa en el tercer trimestre

porque no se le haya dicho qué es lo que pasa pues que el gobierno necesitaba plantear unos datos de crecimiento muy elevados para poder establecer el relato porque los presupuestos señorías ya no se han convertido en un cuadro de ingresos y gastos se han convertido en un relato entonces el relato es

y que por tanto habrá mucho dinero para gastar en políticas públicas luego ya nos encontramos con los problemas no se crece tanto la inflación está disparada el dato del paro

tenemos particulares dificultades para poder ejecutar finalmente los presupuestos pero bueno ese es un problema del mes que viene o del trimestre que viene

elaborado un presupuesto se elaboró un presupuesto con datos como mucho de agosto se le fue advirtiendo al gobierno pero en este caso hizo caso omiso tampoco quiero profundizar demasiado en la materia pero otro dato de la máxima actualidad la inflación

claro qué implica una inflación alta hombre para un gobierno al principio una inflación alta implica que va a aumentar la recaudación efectivamente hay un pequeño efecto que es el aumento de la recaudación a corto plazo sobre todo porque crea una subida

de tirada nacional establece más o menos una subida encubierta de los impuestos directos del irpf pero claro esto es algo

de los impuestos indirectos a lo que voy es que esto va a crear una reacción en cadena y el siguiente episodio que ya lo estamos viendo

es evidente si tú tienes una inflación del seis y pico por ciento pues tú quieres que tu salario por lo menos se quede en la misma cantidad porque si no estás perdiendo poder adquisitivo y qué está pasando aquí

vamos a ir perdiendo poder adquisitivo pero a marchas forzadas

por no hablar de la merma en las exportaciones etcétera en fin que además en euskadi pues hay una industria que tiene

y eso se verá bastante afectado yo quiero ser honesto también y sincero con todos ustedes

muchos de estos elementos o casi todos los elementos que pueden incidir en la inflación no son culpa de él evidentemente

no le vamos a echar al señor azpiazu la culpa también de que la inflación esté altísima

ese tipo de cuestiones se ha perdido la oportunidad con estos presupuestos de corregir de verdad de corregir de verdad una serie de cuestiones y de establecer una serie de políticas

tenemos un problema muy serio con la ejecución presupuestaria un problema muy serio con la ejecución presupuestaria lo hemos dicho y yo lo he dicho hasta la saciedad en esta tribuna tanto lo he dicho que hombre yo creo que ya el gobierno lo último que ha hecho ha sido la modificación también un poco así por detrás de la ley del tribunal de cuentas

van a mandar las liquidaciones desde el año dos mil nueve desde el año dos mil nueve señor azpiazu tela

al tribunal de cuentas está bien muy bien yo le aplaudo esta decisión pero hombre yo creo que hemos tardado un poquito mucho desde el año dos mil nueve hasta ahora

y sobre todo yo creo que aquí se han intentado anticipar a la crítica que le íbamos a hacer desde la oposición yo por lo menos

el otro día señor azpiazu le decía yo aquí en esta tribuna una interpelación que hombre prever poner como elemento estrella de los presupuestos que va a haber mil seiscientos millónes

en inversiones sabiendo que más o menos llegamos a un cincuenta por ciento de la ejecución y entonces señor azpiazu se sube la tribuna

claro yo me quedé afortunadamente tiene un buen equipo de comunicación que

a través de unas rápidas notas de prensa acaba contrarrestando un poco la gran noticia gran titular con el mal menor en este caso que era hombre que tenemos unos mil millónes en excedentes que es un poquito menos porque vamos a usar en estos presupuestos ya veremos

vamos a quitar eso de que no somos capaces de ejecutar ni el cincuenta por ciento de las inversiones pero claro eso es grave porque si ya el propio consejero de economía prevé que es no vamos a llegar al cincuenta por ciento hombre yo creo que esto ya es una cuestión complicada es una cuestión complicada

es que no es de él la falta de ejecución de las inversiones no es de su departamento es de los compañeros que se sientan en el consejo de gobierno

a que ejecuten de verdad porque son departamentos que tienen problemas de ejecución luego hay triquiñuelas presupuestarias tienes una inversión en vez de hacer la licitación etcétera utilizas un medio propio claro los medios propios facilitan todo lo que son las licitaciones ordinarias entonces le adjudicas directamente un contrato

cuándo ejie ponga los ordenadores cuándo el otro medio propio la otra empresa pública

por lo menos contablemente me lo he quitado de encima no hombre no

por eso por esa falta que hay con la ejecución presupuestaria le pedí que por favor estableciera una serie de medidas destinadas a corregir esto porque es que si no

pero de un relato que podía estar un poco en un relato para adultos un relato para niños es que ya estamos yendo al relato casi casi de ciencia ficción

hay una serie de colectivos que son los grandes olvidados ahora haré referencia a alguno de ellos pero

no me olvido de los empresarios de los autónomos según el eustat en una nota de prensa también de ayer mismo la verdad es que no tiene suerte el señor azpiazu con el timing en esta ocasión suele tener bastante suerte pero en esta ocasión no ha tenido demasiada suerte según el eustat a primeros de dos mil veintiuno se contabilizan mil cuatrocientos empresas menos que el año anterior mil cuatrocientos empresas menos que el año anterior claro y luego qué pasa luego pasa que nos vienen ayudas

porque hemos sido incapaces de adjudicarlas se crean supuestos fondos de ayuda a empresarios y luego se establecen unas condiciones tan leoninas que es imposible dicen no no acuda usted a elkargi por ejemplo vas como empresa a elkargi y dicen no es que yo no voy prefiero ir al banco porque si voy aquí me piden que tenga dinero claro yo voy allí porque no tengo dinero

pero no importa por si acaso vamos acumulando y vamos engrosando un fondo que tenemos por ahí guardado por si acaso

veremos a ver qué se hace con ese dinero veremos a ver de qué manera se ingresa en ciertas empresas veremos a ver si es compatible con las ayudas europeas porque esto se salta las excepciones

los gastos e inversiones y ayudas de minimis con lo cual ahí podemos tener otro problema pero bueno eso

para el año que viene y por lo tanto como diría aquel hoy día estamos a otra cosa

que le preocupa al gobierno y que esto es una cosa absolutamente

y esa es la que con una serie de medidas económicas y también con una serie de medidas de tener por ejemplo el euskera prácticamente como un requisito más que como mérito en muchos sectores de la administración pública

sea la industria que siempre va bien y que va especialmente bien y que resiste muy bien los períodos de crisis

que estos presupuestos y que la situación que estábamos viviendo exigía adelantarse porque un gobierno no tiene que reaccionar un buen gobierno un gobierno que no esté agotado un gobierno que no sea el de ya iremos viendo un gobierno de verdad lo que debe hacer es adelantarse a este tipo de cuestiones adelantarse

este tipo de medidas por eso lo de la buena gestión yo la verdad es que no lo veo por ninguna parte llegamos al cuarto punto

y el tercero que sería el político todo presupuesto señorías no es solamente una previsión económica

presupuesto señor gordillo es una previsión pre visión lo dice así además pre visión pero luego

de ahí la frase de ya iremos viendo pero luego vamos viendo y luego lo vamos adaptando entonces bueno pues cada tres meses usted querría que lo hiciera cada mes pero lo hago cada tres meses hombre me gustaría que acertara un poco más sobre todo porque como falla todos los años de la misma forma

decía que un presupuesto no es solo una previsión económica de ingresos y gastos es que es mucho más los presupuestos son la expresión económica

de los esfuerzos y sacrificios que también exigimos y se exige a los ciudadanos para financiar los costes de las políticas públicas y las necesidades colectivas

como diría aquella ministra compañera mía por cierto de gremio que el dinero no es de nadie gestionamos el dinero que no es de nadie no no el dinero del contribuyente del que

para el bien común pero es que además el presupuesto es una visión del esfuerzo que le estamos pidiendo a los ciudadanos desde dos puntos de vista en primer lugar desde el punto de vista de los impuestos que les estamos exigiendo

el coste de oportunidad o la decisión que toma un gobierno de favorecer a un colectivo en detrimento de otro porque evidentemente no hay dinero siempre para todos y cuál es el proyecto

esto se está haciendo un poco al revés primero se ha hecho la nueva mayoría con el grupo eh bildu lo cual nos puede anticipar un poco ver por dónde van a ir los tiros

y ahora veremos cuál va a ser el proyecto político el proyecto político económico nosotros aquí estamos ciertamente preocupados porque

regresivas el gobierno vasco por ejemplo en la práctica está subiendo los impuestos e impide la reducción de la presión fiscal

que nos daría tanto margen de maniobra en esta situación como puede ser el concierto económico se está desaprovechando hay comunidades autónomas que tienen muchas menos competencias fiscales que están sin embargo aumentando la recaudación bajando los impuestos tela eh pero oiga

que tampoco voy a ir al detalle lo tienen también en el texto sobre nuestra enmienda a la totalidad pero aquí lo que se ha visto es que

voracidad recaudatoria que es importante lo hemos visto con la ley de aportaciones

en detrimento de diputaciones y de los ayuntamientos hombre ahí se puede decir no en realidad eso es para constituir un fondo que luego ya repartiremos bueno sí pero por si acaso

sobre el ingreso lo cual es interesante el concierto económico

no deja de ser interesante ese dinero que le sobra al gobierno vasco del que

es un dinero insisto que es de todos es un dinero que no está produciendo ningún tipo de rendimiento a diferencia de la deuda que hemos pedido

en cambio ese dinero que tenemos ahí apalancado pues no está produciendo ningún tipo de rendimiento

en muchos casos del gasto corriente y quedan sin ejecutar las inversiones

evitar gastos y reducir gastos en ciertas cuestiones hombre estar aquí pagando ahora

representaciones en el exterior hay que justificar muy mucho hombre la oficina de bruselas que por cierto tanto que se quejan con la erosión competencial la oficina de bruselas fue una sentencia del tribunal constitucional ponente luis lópez guerra por cierto en la que se estableció que las comunidades autónomas oiga pueden tener representaciones perfectamente en bruselas eso puede tener

establecer ahora pues una representación exterior en parís

o financiar la euskaldunización en francia pues hombre seguir aumentando las partidas de la etb pues hombre

pues hombre no lo sé nosotros lo que proponíamos es aprovechar también para evitar duplicidades armonizar o sobre todo evitar esos solapamientos que tienen un coste anual ya lo estableció el gobierno

informe del que por cierto no hacen más que renegar últimamente y permitiríamos ahorrar una cantidad importante de dinero

reformar la administración de verdad pero no hacer cambios cosméticos como se están pretendiendo últimamente con proyectos de ley que por cierto vienen casi del año dos mil quince sino hombre lo que habría que hacer es reformar realmente la administración

pues proponíamos una reasignación de partidas importante un acuerdo interinstitucional entre el gobierno vasco las diputaciones incluso vinculando también a los ayuntamientos para que hubiera una reforma fiscal que redujera la presión tributaria sobre las familias y los autónomos y las empresas es que aquí el gobierno vasco

tiene una idea y es que ellos gestionan mejor que los ciudadanos esa es la única conclusión lógica que se deriva de la situación en la que estamos seguir acumulando excedentes

que gestionan mejor el dinero que los ciudadanos pues hombre yo creo que esto no debe ser así

pero como les decía antes mucho me temo que aquí el señor azpiazu sabe también más cosas de las que muchas veces nos puede contar

porque la crisis ya está afectando a españa de hecho a las cifras macro al menos y lo que entiendo que querrá hacer en el futuro

públicas pues hombre claro tienes para medio pero es no es buena gestión eso no es más que

gestionamos nosotros mejor que los ciudadanos señor gordillo no sea usted pesado

esa incorporación de los remanentes nosotros la proponíamos insisto a lo largo de la legislatura porque también entendemos que en un año es imposible o

un periodo de tiempo razonable para hacer todas las reformas que entendemos que era necesario hacer también pedíamos un compromiso con la ejecución presupuestaria es que es mejor establecer en el presupuesto la cantidad real que tenemos capacidad o que tiene capacidad el gobierno para ejecutar

que es poner el doble o el triple en algunos casos y luego ser incapaces de ejecutarlo no me olvido del gran proyecto el proyecto del tav del ave o como lo quieran llamar

no solamente las diferencias que hay entre socios que están afectando también

sino que estamos demostrando como comunidad autónoma vamos a ser la última yo creo

cada vez que sale el tema lo único que parece preocupar a los socios del gobierno es el tema de las encomiendas de gestión para ejecutar la parte que les corresponde

esa es la grandísima obra que hay pendiente y eso es algo que también hay que hacer no y sobre todo yo creo que también aquí

para poder cubrir los costes que va a suponer esta infraestructura tan importante nosotros proponíamos enmiendas que han sido rechazadas por todos los partidos aquí presentes concretamente para los soterramientos por ejemplo en vitoria y en bilbao no y sobre todo lo que queremos es que exista un acuerdo interinstitucional para que este proyecto avance no ha sido tampoco posible

cuyo director por cierto ha dimitido porque ve que es más atractivo presentarse a una oposición que seguir siendo alto cargo del gobierno aunque en la práctica depende en qué partido estés acaba siendo lo mismo pero bueno

establecimos y proponíamos un plan de apoyo a las familias y una modernización de las políticas sociales con importantes incrementos las partidas de apoyo a las familias no solo

la ejecución que ha tenido ha sido muy muy inferior

el propio gobierno también proponíamos lo que se está demostrando que debe ser la prioridad del gobierno que es el refuerzo de la atención primaria la adquisición también de material sanitario y la creación de partidas específicas para contratación y consolidación del personal al servicio de osakidetza en definitiva conciliar también la vida laboral y familiar

han parecido si no insuficientes pues sí que han recibido todo tipo de críticas por parte de los grupos del gobierno pero en lugar de eso lo que nos hemos encontrado ha sido

sino sobre todo la falta de autocrítica para darse cuenta es una oportunidad perdida es otra cada ley que llega al parlamento es casi una oportunidad perdida y esta ley presupuestaria es otra oportunidad perdida es otra oportunidad perdida señorías porque no acomete las reformas o no establece las condiciones para

en síntesis es un presupuesto que no está bien calculado no tenemos garantías de que se vaya a ejecutar y no acomete

recursos materiales profesionales y sobre todo una apuesta clara

primaria pueda desarrollarse bajo unos niveles de calidad aceptables

desde esta tribuna sí quisiera manifestar toda mi solidaridad con las y con los trabajadores

el sistema de salud tengan ahora que luchar precisamente por sus condiciones laborales dignas

dada la situación crítica que atravesamos que recoger sus demandas laborales sea una condición necesaria para garantizar el derecho

y es que la otra cara de esta protesta está al otro lado del teléfono que está intentando somos cualquiera de nosotras intentando que le den la cita

que le ha salido o gente que necesita prescripción médica para paliar un dolor intenso

a la que no se está pasando consulta o gente que precisa urgentemente que le den una baja médica por depresión directamente

en estos dos años después del inicio de la pandemia el derecho a la salud de las vascas y de los vascos no está debidamente garantizado hace siete años lehendakari el señor urkullu en octubre de dos mil catorce se acercó a los trabajadores

y que denunciaban precisamente los recortes y

aunque en ese momento no se previera o no se viera de esa manera las personas que allí estaban concentradas estaban advirtiendo estaban avisando de que si el gobierno no apostaba decididamente no apuesta decididamente por nuestro sistema de salud pública

y las consecuencias serían peores esta

y lo que ha hecho es que nuestro sistema de salud sea cada año más débil y con ello también salud está siendo cada vez más débil lamentablemente esto no ha cambiado desde que empezó la pandemia se ofrecen parches medidas algunas medidas pero

recortes de servicios se podía haber aprovechado

para invertir más y mejor en salud o el marco de los presupuestos generales del estado también para incrementar plantillas para contratar de forma definitiva más personal sanitario y desgraciadamente no se ha hecho así esto muestra también parece mostrar que al contrario de lo que se nos ha explicado tantas veces y es que las políticas austericidas fueron impuestas por los gobiernos de españa

también el propio partido nacionalista vasco ha sido uno de los principales artífices de

no es capaz de responder ante situaciones de estrés y esto lo convierte en un sistema sanitario débil y convierte nuestra salud también en algo débil nosotras hicimos en todo caso una lectura minuciosa y crítica del conjunto de la ley general de presupuestos y también de los tomos

a nuestro juicio no debían aceptarse no eran buenos eran elementos que dejaban en evidencia que se trataba de unos presupuestos

que por salvar por ejemplo la sanidad contención de gasto de las administraciones públicas elementos nocivos para la negociación colectiva de los trabajadores del gobierno vasco y hay otros indicadores claros de que lo único que cambiaba realmente a través de estos presupuestos en este sentido era la retórica del gobierno en todo caso aun así y dadas las circunstancias de extrema gravedad en las que

incluido el propio sistema público de salud está en juego también nos sentamos a negociar porque nos parecía que era necesario forzoso recuperar los más de cuatro mil sanitarios y sanitarias que llegaron al rescate de osakidetza en los momentos

y de los que el gobierno había decidido prescindir no lo hemos dicho en otras ocasiones no entraron a valorar ni siquiera entraron a valorar esta propuesta y se limitaron a tacharla de irreal irrealizable

ante la peor crisis sanitaria desde la llamada gripe española en mil novecientos dieciocho no es no era irrealizable es necesario lamentablemente

imperiosa necesidad y absolutamente urgente lo es

el gobierno vasco debe tomar decisiones que vayan en consonancia con las prioridades de la ciudadanía y yo creo que en estos momentos la prioridad de nuestra ciudadanía

el gobierno nos está sigue desplazando la responsabilidad de la propagación del virus en la ciudadanía en nuestro comportamiento individual y nosotras siempre décimos que

y que no está actuando a nuestro entender a la altura de lo que exigen las circunstancias

responsable que el cuatro de octubre por ejemplo fueran despedidos setecientos cincuenta de los ochocientos rastreadores no es responsable más que como dirigentes de un gobierno parecen parece como si el poder público fuera una multinacional

ez da bide ona este presupuesto en definitiva consolida la falta de inversión en sanidad pública altas tasas de temporalidad la sobrecarga sistemática de trabajo

de medios humanos y materiales los recortes de las condiciones laborales la privatización de servicios y la inacción ante el colapso de la atención primaria esto es lo que se está apoyando pero además este fenómeno que estoy describiendo es extensible también a otros ámbitos de la administración ámbitos que durante largos años se han ido erosionando

no es sino otro paso más en esa dirección implica la consolidación de una forma de gobernar que va en contra de los trabajadores del sector público

en definitiva de los derechos de la ciudadanía vasca si hablamos de educación también por ejemplo

en el eje del sistema educativo la educación pública y poder asegurar de esta manera la igualdad de oportunidades y la cohesión social

para quedar bien ante la ciudadanía porque se supone que es lo que hay que defender que es lo políticamente correcto para nosotras defender la educación pública y apostar por ella como eje vertebrador del sistema educativo exige compromisos

recursos para que este derecho no continúe siendo una fuente de segregación teniendo en cuenta

necesidades educativas las condiciones económicas de la población y revirtiendo los recortes de los últimos diez años por eso también a la negociación presupuestaria llevamos lo que consideramos

una propuesta ambiciosa con el objetivo de invertir en infraestructuras para los centros públicos para garantizar también la gratuidad de la educación de cero a tres años y en definitiva para llevar a cabo un plan serio

y en favor de la inclusión escolar otra de nuestras propuestas en el marco de la negociación fue la creación de una empresa pública de energía una empresa pública que permitiera a los vascos y a las vascas desenchufarse del oligopolio energético y que a su vez

hemos leído recientemente con sorpresa el criterio desfavorable del gobierno pero sorpresa no porque el gobierno estuviera en contra que eso ya nos lo podíamos

para presionar en madrid la limitación de los beneficios caídos del cielo

que hubieran leído otra proposición de ley y no la que nosotras presentamos

afirmaba por ejemplo que el eve ya cumple esta función

el eve se mantiene la nueva empresa que proponíamos sería una entidad adscrita al eve

o la sociedad de hidrocarburos de euskadi al parecer no hay

dentro del eve una empresa pública del gas pero sí se ve como un problema que exista una empresa

y comercializar a la ciudadanía energía renovable en la actualidad creemos que el eve solo favorece a unas pocas empresas que centralizan todo el poder para generar y comercializar la energía y ahí están los acuerdos con iberdrola grupo mondragón o la alianza del hidrógeno y lo que nosotras nos preguntamos es dónde está el acuerdo para abaratar el precio a la ciudadanía de euskadi este gobierno se ha empeñado en

diciendo que es imposible abaratar el precio de la luz de un día para otro pero es que nosotras

no es posible a lo que aspiramos y esta ley es un instrumento para ello aspiramos a avanzar hacia la soberanía energética para que eso algún día pudiera ser posible de hecho esto más fácil de ser posible si el gobierno vasco hubiera planificado con tiempo un despliegue de energías renovables hace años pero no se hizo y ahora tampoco se hace por qué y no es porque nuestra

tenemos la sensación de que ustedes actúan más bien como representantes del oligopolio energético hablemos de política social

famosa frase que dice que una cadena es tan fuerte como lo es

incluiría otra que afirma que el valor de una sociedad se mide por el trato que da a las personas más vulnerables

para hacer una pequeña reflexión sobre las políticas sociales y me estoy refiriendo en este caso a las relativas a la protección social específicamente

política social en la que van destinados al parecer ocho de cada diez euros que son prácticamente casi todas las competencias

sino que estoy hablando de aquellas políticas que suponen el grueso de transferencias a la ciudadanía con una finalidad redistributiva de la riqueza

de las políticas de protección social para nosotras eso es no dejar atrás a nadie y en repetidas ocasiones y lo vuelvo a decir para que quede claro y la ciudadanía esté al corriente de todos los recortes que se han producido en esta materia en este presupuesto porque se han producido recortes algunos datos

hay un recorte de cinco millónes en las ayudas de emergencia social

hay un recorte en acción social de treinta y cuatro millónes de euros hay un recorte en servicios sociales de más de dos

hay recortes en ayudas a familias para la conciliación y a la crianza de más de cuatro millónes y como colofón tan solo el cero coma cuatro por ciento

específicas de igualdad se pueden maquillar y lo harán como quieran estos recortes pero es

y que es el número de perceptores el que determina esta ampliación

visto lo visto como siempre tememos que va a ser la interpretación restrictiva

lo que acabará reduciendo la prestación de este derecho

es acabar con la pobreza en euskadi no es una herramienta para dirimir quién tiene derecho a vivir dignamente y quién queda relegado a la exclusión social por eso con la aprobación del ingreso mínimo vital en el estado teníamos la oportunidad de ensanchar este derecho y de hacer que llegará

aquí pues para ahorrar para recortar

eso es lo que se ha hecho y no otra cosa además

hacemos en base a qué asume el gobierno vasco que habrá en esta ocasión menos solicitantes de esta prestación porque de hecho

indicadores de arope que es la principal referencia de pobreza y de exclusión social la tasa de riesgo de pobreza de pobreza severa y de la brecha de pobreza se han incrementado de la crisis no todos no todas salimos igual las brechas sociales se incrementan los ricos

y estos presupuestos se han reducido significativamente

los mecanismos de protección social existentes desgraciadamente estos presupuestos

en conclusión necesitamos abrir horizontes de futuro

necesitamos planes de desarrollo económico territorial y ordenado para alcanzar el pleno empleo y para ordenar una economía que es caótica y que es excesivamente dependiente

del exterior los presupuestos son la principal herramienta para garantizar la salud pública

para asegurar la recuperación económica basada en la igualdad y también para abordar una transición ecológica que no puede esperar más

presentado por el gobierno vasco y que será hoy aprobado con los votos favorables del grupo nacionalista del grupo socialista y también de euskal herria bildu no responde a ninguna de estas exigencias el año dos mil veintidós no va a ser un año fácil y el descontento social seguirá creciendo

aquí sí en el capítulo de seguridad zuen aritzeko modua ikusi

egun on eskerrik asko mahaiburu andrea el debate de hoy no deja de ser una formalidad parte

precisamente por la mayoría absoluta que tienen los partidos que sustentan al gobierno

gutxi batzuk aukeratzea ezartzen baitute en una situación normal podríamos incluso entender que con una mayoría absoluta nada

el mismo guion donde cada vez se trasvasa más dinero de los presupuestos públicos

que manejan los fondos públicos generando sobrecostes en la administración a cambio de trabajos y de condiciones de trabajo precarios y precarias para los trabajadores o que sean incapaces ante la mayor crisis energética de la historia de impulsar proyectos energéticos renovables desde lo público

esa subida escandalosa de los precios pero hoy casi en dos mil veintidós un año y nueve meses después del shock del covid diecinueve y una vez que afortunadamente y aunque sea de forma temporal se han suspendido las sacrosantas normas de la estabilidad presupuestaria

no entendemos qué sentido tienen unos presupuestos que ahorran dinero y que dejan de invertirlo en políticas públicas y en generar empleo público

que no contemplan planes estructurales contra la lacra de la siniestralidad laboral que solo este año en lo que va de año ha subido un diecisiete por ciento y que se ha llevado solo este año más de treinta vidas por delante en euskadi aurrekontu osoaren ehuneko

apustua unos presupuestos que no invierten en empresas estratégicas para euskadi para que el gobierno vasco participe en las mismas ayer se perdió un nuevo trozo de euskaltel con el traslado de su centro logístico dónde está señora tapia el famoso arraigo que iba a mantener euskaltel en euskadi non dago

del sistema educativo en euskadi la segregación escolar que no solo es un título la segregación escolar tiene nombres y apellidos muy diversos además

supone que los hijos y las hijas de las familias más aventajadas parten con kilómetros de ventaja

a la misma meta eso es la segregación escolar en euskadi y por desgracia somos líderes en el estado español y la tercera en europa

ez finkatzeko unos presupuestos que como ha dicho mi compañera

llegan tarde para esta sexta ola a la que llegamos

totalmente desbordada y que sigue dando a pesar de ello el doscientos por ciento todos los días unos presupuestos que se van a aprobar

para el covid tal y como proponíamos y seguimos proponiendo desde elkarrekin podemos izquierda unida y con una atención primaria que ya estaba deteriorada totalmente exhausta y con falta de medios unos presupuestos que no abordan la necesidad de aumentar la capacidad y la financiación para poder hacer

privada señora sagardui ayer las trabajadoras de osakidetza

en las puertas de los ambulatorios que antes esenciales ahora invisibles

trabajo señora sagardui y ayer

se repartía esta circular en los hospitales de euskadi y concretamente por ejemplo en el de basurto

y voluntarias trabajadores voluntarios y voluntarias para afrontar

podemos entenderlo y la vacunación acaso no estaba prevista la vacunación y por qué se pide personal voluntario y no se contratan más trabajadores porque se han despedido a más de cuatro mil personas toca cuidar señora sagardui señor a quien nos está cuidando a quien nos lleva cuidando tanto tiempo toca reforzar

a la calle toca creerse además el famoso

están fuertes y que además esos servicios públicos se fortalecen con el trabajo

seamos igualmente libres e igualmente fuertes y no

por todas estas razones y porque pensamos que euskadi que la gente trabajadora de euskadi puede tener y se merece unos presupuestos mejores votaremos que no a los mismos

gracias presidenta lehendakari consejeras consejeros señorías

estamos ante un presupuesto aún enmarcado en una situación de pandemia pero a diferencia del ejercicio dos mil veintiuno con una previsión clara de crecimiento y recuperación económica y con nuevas incorporaciones económicas provenientes de la financiación europea para la reactivación económica

así como para impulsar las reformas estructurales que necesitamos para que ese crecimiento sea sostenible y equilibrado atendiendo a los sectores y personas que más lo necesitan además es un presupuesto que ha conseguido aunar voluntades y mayorías elevadas en torno al mismo

que requerirá en su momento la correspondiente revisión los fondos europeos vinculadas al plan de recuperación next generation y el endeudamiento

mixta de concierto económico por tanto estos presupuestos recogen el compromiso de gobierno de proseguir con una política presupuestaria

de los recursos públicos y la sostenibilidad de las finanzas públicas procurando el cumplimiento de los

y de deuda quince coma seis por ciento del pib acordadas en la comisión mixta del concierto económico

también la flexibilidad que otorga la comisión europea al suspender de forma excepcional las reglas fiscales nos permite maximizar la inversión pública

disponibles señor martínez recursos que provienen del buen comportamiento de la economía y la recaudación un incremento del catorce por ciento a noviembre del dos mil veintiuno pero también de los acuerdos alcanzados en la comisión mixta del concierto económico en el capítulo de los gastos

pretenden el relanzamiento económico de euskadi y uno de sus ejes principales

lo que supone un incremento del cincuenta por ciento del capítulo de inversión respecto a los presupuestos actuales junto con esa gran apuesta por la inversión pública

y mantiene su esencia al garantizar y mejorar las políticas sociales correspondiendo el setenta y siete por ciento de este proyecto a las mismas salud vuelve a ser el departamento que cuenta con el mayor presupuesto

que supone ciento sesenta y ocho millónes de euros más que en dos mil veintiuno la educación continúa siendo uno de los motores esenciales de los presupuestos en dos mil veintidós dispondrá de tres mil doscientos treinta y cinco millónes de euros el presupuesto más alto

se sigue reforzando la educación de cero a tres años las políticas de bonificación de cuotas y tramos a las familias que más lo necesitan y las políticas de inclusión se incrementa notablemente la partida de comedores escolares y se contemplan acciones muy concretas

así como la financiación de la upv con inversiones en nuevas infraestructuras y en la política científica con un claro compromiso por la formación del personal investigador el departamento de trabajo y empleo es el tercero en cuantía con novecientos treinta y seis coma dos millónes de euros

en materia de empleo la revisión de las previsiones apenas trae cambios respecto a las de septiembre la evolución favorable del empleo

que se situará en el diez por ciento este año de media anual y bajará hasta el nueve coma dos por ciento el próximo en cuanto a la calidad del empleo que se genera aún es débil por la alta temporalidad y la parcialidad no deseada y ambos asuntos se están abordando dentro del marco competencial de la mesa de diálogo social que dirige

el acuerdo de un nuevo marco laboral en nuestro ámbito competencial se ha diseñado la estrategia vasca de empleo dos mil treinta con la participación de los agentes sociales

esta estrategia es el marco y la hoja de ruta que orientará todas las acciones en materia de empleo para casi una década por tanto dentro del ámbito laboral

con la concertación social creando también la mesa de trabajo autónomo con el emprendimiento colectivo donde destaca el proyecto coopera con la brecha salarial

sobre brecha salarial con la inspección de trabajo con el refuerzo de la plantilla y con la mayor dotación de recursos materiales para facilitar las visitas a los centros de trabajo

de la prevención de riesgos laborales con el fin de aflorar las patologías laborales y enfermedades de origen laboral que hoy en día no son fáciles de detectar o la creación de un observatorio vasco para la prevención de riesgos laborales

la mejora del empleo y la incidencia económica del ingreso mínimo vital ajustan la dotación presupuestaria prevista

ampliables si fuera necesario a su vez planificación territorial vivienda y transportes cuenta con un presupuesto que sin la y vasca y la variante sur suponen un incremento porcentual del catorce coma cinco por ciento respecto al dos mil veintiuno y aborda desde sus distintas áreas funcionales la regeneración

dos mil cincuenta la culminación del desarrollo reglamentario de la ley de vivienda con especial atención a la aprobación del decreto del derecho subjetivo de vivienda para garantizar una respuesta integral a las necesidades de vivienda con el fomento del alquiler asequible la emancipación de las y los jóvenes y el incremento

y también la interoperabilidad de los títulos de viajes existentes en euskadi en todos los medios de transporte público y la licitación de las líneas cuatro y cinco del ferrocarril metropolitano de bilbao dentro del ámbito de las infraestructuras de transporte ya que el gobierno vasco tiene un compromiso firme tanto con la movilidad sostenible

y turismo comercio y consumo incrementa su presupuesto hasta los cincuenta y dos coma uno millónes de euros estos presupuestos contemplan la recuperación del comercio el turismo y la hostelería

contando además con aportaciones de fondos europeos que van a permitir una capacidad de gasto del departamento

un cuarenta y seis por ciento de esa capacidad de gasto estará destinada a inversiones centrando este esfuerzo inversor en los recursos turísticos en zonas de actuación preferente en el turismo sostenible y en el comercio competitivo

en un consumo responsable por tanto se visibiliza cómo se ha establecido una estrategia de gasto público

y hacerlo con los pilares más competitivos y con mayor cohesión social abordando los retos de la transformación energético ecológica

y la necesidad de reforzar la resiliencia de nuestro estado de bienestar es un presupuesto que pone en marcha las bases de la reactivación y de la transformación

son coherentes con el contenido del pcti euskadi dos mil treinta

con la estrategia vasca de empleo dos mil treinta el plan estratégico de empleo dos mil veintiuno dos mil veinticuatro plan estratégico de transición energética y cambio climático dos mil veintiuno dos mil veinticuatro plan estratégico de economía circular y bioeconomía

estrategia energética de euskadi dos mil treinta estrategia contra el cambio climático dos mil cincuenta

estrategia para la transformación digital de euskadi dos mil cincuenta plan de desarrollo

e internacionalización dos mil veintiuno dos mil veinticuatro y por tanto con el programa

fondos europeos todos estos planes tienen por objetivo el relanzamiento económico de euskadi y la recuperación del empleo

de un proceso de recuperación económica y social y afrontando los retos de las tres transiciones por tanto

los retos de país que usted ha mencionado los socialistas vascos pensamos que el esfuerzo realizado por el gobierno vasco en la negociación presupuestaria ha sido importante ofreciendo mejoras y nuevas partidas económicas en salud en cuidados de las personas en igualdad y violencia de género en educación vivienda

en medio ambiente y eficiencia energética y en protección e inclusión social

al grupo elkarrekin podemos izquierda unida con compromisos en salud educación medio ambiente vivienda y empleo

más recursos para la implantación de la estrategia de atención primaria más recursos para la ampliación de los servicios de salud bucodental en colaboración con el ministerio de sanidad compromisos con inversiones en centros educativos y bonificaciones a las matrículas de cero a tres años compromisos con el empleo

lanbide sobre formación en nuevos nichos económicos para personas desempleadas o las nuevas plazas de

compromisos en inclusión social en ayudas sociales para gastos energéticos en emancipación juvenil en política de transición hacia nuevos modelos de cuidados

planteándose además la activación de los noventa millónes de euros en dos mil veintiuno del fondo de sostenibilidad energética para los ayuntamientos vascos compromisos en vivienda como incremento para la compra de vivienda pública para alquiler social o plantear

medidas fiscales para la contención de precios de alquiler y plantear un sistema de control de precios de alquiler privado cuando la ley estatal lo permita

se ha excluido de estos compromisos y han preferido presentar una enmienda a la totalidad rechazando medidas que la propia coalición

y que suponía reforzar las políticas y acciones del gobierno vasco contempladas en los presupuestos de euskadi para el dos mil veintidós presupuestos que no recogen

comisiones por las que ya llevamos pasando y trabajando en opinión de los socialistas unas enmiendas por importe de quinientos millónes

que se compromete con lo público con las redes de protección social con la movilidad sostenible

con el emprendimiento con el empleo seguro en definitiva con todo lo que ha puesto en riesgo la pandemia no representa ningún proyecto alternativo y pienso

izquierda unida ha desaprovechado una oportunidad muy valiosa para haber sumado en una situación tan importante como ustedes dicen para garantizar la salud

por eso pienso que se han excluido y lo justifican diciendo que hay recortes pero eso saben que no es cierto ni se sostiene ya este tipo de argumentos

porque estas cuentas van a contar con un respaldo del ochenta por ciento de esta cámara en cuanto al contenido del acuerdo las medidas pactadas inciden en la línea que ya se venían trabajando y que formaba parte del propio espíritu del programa de gobierno

hablamos de medidas para conseguir empleos dignos y de calidad en una línea que está siendo troncal en el departamento de la vicelehendakari idoia mendia regular los precios de alquiler

explorando el departamento de vivienda reforzar la atención primaria

combatir el cambio climático o aumentar las partidas de protección de las personas en riesgo de exclusión social en definitiva medidas y partidas que valoramos positivamente

y encajan con el espíritu y la misión de este gobierno en cuanto a las enmiendas presentadas por el grupo vasco popular ciudadanos

las hemos votado pero no en cuantía económica tampoco representan ningún proyecto en sí mismo alternativo al proyecto de presupuestos

o de reasignación de importes de hecho usted señor gordillo ni las ha mencionado ni explicado hoy aquí pero yo sí lo voy a hacer lo voy a hacer con algunas de ellas

con el sector público o con el empleo en políticas de

para hacer frente a los nuevos retos con programas específicos dirigidos a la infancia y

con novedades en las líneas de ayuda a la conciliación para excedencia y reducción de jornada para el cuidado de personas con dependencia o en situación

o las ayudas a la conciliación para la concertación de personas trabajadoras

o hijas menores de catorce años la descentralización del servicio de mediación familiar la extensión del programa de apoyo a familias monoparentales la equiparación de permisos en unidades convivenciales monoparentales y el observatorio de familia y de infancia y adolescencia entre otras medidas

cabe destacar la tramitación del proyecto de ley del sector público vasco que establece entre otros asuntos principios y normas comunes a su dimensionamiento y transformación así como a su funcionamiento como servicio público proponiéndose la creación de la comisión interinstitucional

dimensionamiento del sector público vasco que estudiara y formulará propuestas para el tratamiento de posibles ineficiencias solapamientos o

entre los sectores públicos y en cuanto a la reforma necesaria e imprescindible de lanbide la reforma está en marcha presentada públicamente en enero informada personalmente a los grupos por parte de la vicelehendakari y aprobada por el consejo de administración en el mes de octubre tras recibir sus aportaciones esta reforma se refleja también en proyectos pilotos innovadores como

aukeraberri para rescatar a trabajadores de empresas en crisis o la unidad de empresas para acercar los servicios de lanbide a las empresas así como los nuevos programas de jóvenes generacional con todo podemos concluir que se orientan los ejes principales de estos presupuestos el incremento del presupuesto en políticas públicas los más de mil seiscientos millónes de inversión pública el firme compromiso

los ocho de cada diez euros destinados a gasto social el mantenimiento del programa covid al cien por ciento en salud y educación y la apuesta inequívoca

por todo ello nos alegramos de haber llegado a través del diálogo y la negociación al acuerdo con el principal grupo de la oposición eh bildu que refuerza aún más este proyecto presupuestario y lamentamos una vez más que el resto de grupos de la oposición

más cuando en sus enmiendas entendemos que no han presentado ningún proyecto alternativo eso sí es una oportunidad perdida eskerrik asko eskerrik asko pérez andrea

hemos pasado de una época de cambios a un cambio de época marcado por la convergencia de diversas crisis

convive con la aceleración de los problemas asociados a la crisis climática estamos ante un serio toque de atención que nos advierte

nos está conduciendo a un punto de no retorno y que nos encontramos ya al borde del abismo bai pandemiak bai trantsizio ekologiko eta digitalak

berebiziko garrantzia duen akordio bat bultzatu dugulako en los dos ejercicios presupuestarios que quedan en esta legislatura el presupuesto público dedicado a la

además el gobierno establece por primera vez el objetivo de intentar alcanzar el tres por ciento de inversión en dos mil veintiocho

se establece el objetivo de situar nuestro país en primera línea de la ciencia y de la investigación horregatik guztiagatik zalantzarik gabe esan dezakegu

estructuras mermadas e incluso desmanteladas mensajes incoherentes y no unificados

que nunca ha servido de nada ni siquiera para ustedes kaosa

osakidetza eta osasun publikoa egoera berrira egokitzeko lehen urratsa izatea palanka bat izatea esperamos que la inversión de treinta millónes para reforzar la atención primaria sea el principio de un nuevo camino un punto de inflexión inoiz baino gehiago lehen esaten nuen bezala

eta guretzat hori ere pena da el acuerdo alcanzado en relación al bienestar energético supone por un lado un logro conceptual porque pasamos de hablar de pobreza energética a hablar del bienestar energético y creo que eso es importante y por otro lado es una partida que casi revierte los recortes en las aes

de las grandes empresas energéticas y de un sistema

las facturas energéticas en una verdadera transferencia de rentas premiazko egoera batean gorantz

izan duen horrelako zuzkidura ekonomikorik la estrategia vasca de personas sin hogar es una estrategia bien direccionada pero que tenía dos problemas fundamentales

es voluntaria y el segundo el no contar con una dotación económica para su desarrollo por eso es importante esta incorporación al presupuesto que va a cambiar el planteamiento para el desarrollo de la estrategia jauzi kualitatibo bat suposatzen du

bi mila hogeita bateko lehen seihilekoan hay que remontarse a mil novecientos noventa y ocho para encontrar una tasa tan baja de emancipación según un estudio del consejo de la juventud gazteriak era endemikoan bizi duen

jai dugu pese a estas incorporaciones este presupuesto sigue muy lejos de lo que necesita este país para afrontar el futuro con garantías no hemos conseguido corregir los problemas estructurales que presenta no vamos a hacer la revolución con lo conseguido

que la respuesta que estos presupuestos ofrecen a determinados ámbitos sea mejor que lo que ofrecía el proyecto original de gobierno

hemos conseguido una serie de compromisos que si bien en algunos casos no suponen más que un paso un paso pequeño que podría haber ido más allá si hubiera habido otra voluntad política tienen el potencial de marcar la dirección del camino por el que transitar en un futuro y abren puertas que permanecían cerradas a cal y canto

el pnv y el partido socialista empiezan a vislumbrar que ese es el camino correcto o si estamos ante una anécdota un destello que mencionábamos el otro día veremos

dinámicas de soliloquio como la que mantiene en la gestión de la pandemia o los fondos europeos veremos si el camino por el que se opta es de verdad por el auzolan

el camino sigue siendo otro el de la imposición para euskal herria bildu al igual que para otros muchos agentes estos presupuestos todavía son insuficientes lo eran antes de que lográramos un acuerdo para abstenernos ante ellos y lo siguen siendo después pero hemos decidido no quedarnos en la mera crítica hemos decidido intentar mejorar

por tres razones fundamentales en primer lugar porque vivimos tiempos complejos de transformaciones inseguridades y también tiempos de pandemia

en este contexto hay que dar una oportunidad a buscar acuerdos que den soluciones y seguridad a las personas

en segundo lugar porque a través del diálogo con los gobiernos hemos constatado la posibilidad de llegar a acuerdos interesantes en aspectos claves que ya hemos desgranado y finalmente porque aunque no hayamos logrado el acuerdo en temas como el de la fiscalidad los cuidados el sistema comunicativo vasco y el mundo cooperativo el ejercicio de debate político

rodeado a la negociación presupuestaria ha puesto el foco y ha dado a estas materias la centralidad que merecen galdera beraz hau da ezohiko

denborak erakutsiko du hori nosotras no creemos en el acuerdo por el acuerdo euskal herria bildu llega a acuerdos siempre que los mismos supongan mejorar la vida

orgullosa por ejercer una política al servicio de toda la ciudadanía una política con mayúsculas una política útil que se aleja de siglas y de intereses particulares y que pone a las personas por delante de todo las personas en el centro de todas las políticas

este partido se siente orgulloso en primer lugar por el esfuerzo de todo el gobierno de todos sus departamentos por presentar unos presupuestos ambiciosos inversores muy importantes por la cuantía pero sobre todo por el acierto en su destino porque gastar todos y todas lo sabemos si hablamos de nuestra economía doméstica gastar es fácil cuando se tiene pero hay que gastar bien no derrochar atender a las prioridades es más complicado hablamos de una buena gestión y es por eso que queremos agradecer a todo el equipo del gobierno vasco el haber conseguido que estas cifras tengan una clara orientación social y unos objetivos asociados al bienestar del conjunto de la población y en especial de aquellos colectivos que peor lo están pasando porque hay que tener recursos sí es importante y sobre todo en el momento en el que nos está tocando vivir pero hay que saber utilizarlos utilizarlos bien desde la eficacia

tienen recuperación transformación progreso servicios públicos protección social todo eso es

a los y las ciudadanas lo que les preocupa es que estos recursos públicos se usen para mejorar sus condiciones de vida y estoy convencida de que este gobierno ha acertado en el análisis

así que sí hoy es un día para felicitar al ejecutivo y para felicitar a toda la sociedad vasca por aprobar los presupuestos del relanzamiento de euskadi estamos ante una excelente noticia y si aplaudiera el trabajo del gobierno en la elaboración de estas cuentas que hoy verán la luz quiero también poner en valor su voluntad de pacto

nos dan este gobierno y las formaciones que le damos apoyo hemos sabido ser flexibles hemos mostrado desde el minuto cero la disposición sincera a sumar y se ha conseguido

y aquello que era bueno para euskadi se ha incorporado hemos visto que ha sido un ejercicio sincero de diálogo y entendimiento con resultados positivos porque si estas cuentas eran buenas

es la herramienta más potente que tenemos para salir fortalecidos de esta crisis para crecer avanzar

esta vez el acuerdo ha sido con eh bildu porque el resto no ha buscado la aproximación pero otros años hemos negociado y acordado con elkarrekin podemos y también con el partido popular

egin duzue han visto ahora que la colaboración siempre es mejor nosotras y nosotros siempre hemos dicho que en la suma está la riqueza

y porque es nuestro deber nuestra responsabilidad porque creemos en el diálogo y lo practicamos porque creemos en la política del acuerdo como elemento transformador de la sociedad

solo bildu ha sido capaz de dar este paso adelante nuestra mano sigue tendida al resto de grupos que hoy no apoyan este presupuesto

es cosa de los y las setenta y cinco que estamos aquí sentadas y que representamos a toda la sociedad a esa sociedad que nos pide alejarnos de la crispación del frentismo de la política de pancarta

con valentía y pensando en el bien común para eso nos han elegido para trabajar en proyectos estrategias y planes que nos hagan avanzar y desarrollarnos si se quiere como hemos visto este año y en precedentes con el resto de formaciones se puede

pero hemos hecho el esfuerzo y se ha conseguido un esfuerzo real y sincero lehendakari jauna

se reafirman en su posición la del acuerdo la concordia porque ustedes este gobierno siempre han tenido un objetivo por encima de todo euskadi y sus ciudadanas

que otros grupos políticos se unan a este camino y que los acuerdos que hoy alcanzamos no sean hechos coyunturales sino cambios permanentes y no sean puramente tácticos porque quien gana es euskadi cada grupo político de esta cámara sabe lo que ha aportado a este país en toda su historia que el partido nacionalista vasco ha sido mucho orain batzuek hori norbegiako sozialdemokrata modernoak direla

duro aunque con algunas luces que nos indican que la recuperación ya ha comenzado en euskadi este año vamos a crecer un cinco coma seis por ciento

tendrán un empleo la tasa de paro será del nueve coma dos por ciento que era el objetivo para toda la legislatura pero nos queda

a las empresas con dificultades a aquellas personas que no han recuperado sus empleos y aquellas que no tienen un empleo digno ni estable empleo sí

que se preocupe por el entorno y por la sociedad por el medio ambiente estamos creciendo ya y queremos seguir haciéndolo hay que generar nuevas oportunidades y hay que estar con quienes peor lo están pasando

paradas de larga duración mujeres jóvenes asumimos esta responsabilidad

dejaremos dos mil veintiuno y nos adentraremos en dos mil veintidós un ejercicio que tampoco va a ser fácil y que estará rodeado de incertidumbres la pandemia sigue y los problemas a los que nos enfrentaremos

que se les ayudará como ejemplo reciente los avales de treinta y cinco millónes aprobados por el gobierno vasco para líneas de financiación a pymes y autónomos la ampliación a siete coma uno millónes de euros de euskadi bono denda el incremento del tres por ciento de la rgi y la prestación complementaria

es un derecho subjetivo las ayudas de emergencia social con incrementos del cuarenta por ciento para combatir también la pobreza energética salud

millónes de euros problemas que iremos superando como lo hemos hecho otras veces con el trabajo de todas y todos y con la implicación de las instituciones

para combatir esta pandemia y posibilitar el relanzamiento social y económico de euskadi hoy diremos sí a unos presupuestos para el futuro de euskadi para transformar euskadi y para ello estos presupuestos deben ser y lo son unos presupuestos humanos centrados en atender las necesidades de la población centrados en la salud la educación

para salud casi ocho de cada diez euros van a políticas sociales y decía

unos presupuestos que sitúan a las personas en el centro de las políticas pertsonak zaindu eta babesten dituenak

señora gorrotxategi si lo ve usted insuficiente se está haciendo una buena autocrítica como ven el departamento de salud osakidetza cuando ha sido necesario

porque la política de contratación siempre ha sido de adecuación a las necesidades de cada momento para conciliar el mejor servicio y la sostenibilidad del sistema sanitario y tal y como lo ha manifestado la consejera seguirá contratando en la medida que existan necesidades y disponibilidad de perfiles sanitarios con un protocolo definido que incluso ha sido premiado

los contrata porque el objetivo de este gobierno y de nuestro partido siempre ha sido mantener y reforzar un sistema de salud público universal gratuito y de calidad ayer mismo veíamos esta apuesta por la sanidad pública en la inauguración del nuevo edificio de servicios generales del hospital universitario de araba

que reforzarán la atención sanitaria de más de doscientos mil personas en este territorio mejoras para las y

para los y las profesionales este es el trabajo constante de este gobierno nuevas instalaciones y nuevos equipamientos para mejorar la salud de todas y todos nosotros

en ningún momento las dificultades a las que este departamento se enfrenta el cansancio de las y los trabajadores porque lo han dado todo y desde aquí nuestro agradecimiento pero haciéndolo con humildad y sabiendo que no hay certezas absolutas en esta pandemia

me apena ver la oposición de ciertos grupos de también los que hoy apoyan este presupuesto apoyando discursos que divulgan el desmantelamiento de la atención primaria

cuidar y proteger a las personas con una atención de calidad cuando así lo valora la ciudadanía

una nota media de siete coma cinco y si esta atención de calidad se puede dar es gracias a sus profesionales a la gestión del departamento de salud y también a este presupuesto avalado por una amplia mayoría y que además ha aumentado a consecuencia del acuerdo en treinta millónes de euros para precisamente eso

a todas y todos nos iría mejor si los esfuerzos los dedicasen a insistir en la vacunación el uso adecuado de la mascarilla y a cumplir las medidas de prevención porque seguro que así la atención primaria estaría menos tensionada

podemos se abstiene en esta enmienda del pp pero rechazan el aumento de cuatro millónes de euros en ayudas de emergencia social acordado con eh bildu el pp propone crear un fondo de formación

pero descontando de las retribuciones de los agentes podemos también se abstuvo en esta enmienda me quiere decir usted que está de acuerdo en que la formación se la paguen los propios empleados públicos está de acuerdo con la eliminación por ejemplo en gobernanza

por cierto cuestión que el pp elimina aquí pero que luego en el senado apoya a través de una enmienda

ciertamente ridícula apoya podemos la eliminación del presupuesto a planes estratégicos para la escuela inclusiva

concertada no sé cómo encaja esto con su lema de la inclusión y el eje vertebrador de la escuela pública que nos acaba de comentar

a todo esto han mostrado su apoyo con su abstención y a nuestros presupuestos no y a las enmiendas acordadas con eh bildu para reforzar la atención primaria para aumentar las ayudas de emergencia social partidas a la juventud

a eso han dicho podemos que no nosotras tenemos muy claro que nuestro voto a estas enmiendas es un no rotundo y no cambiará por estrategia porque somos un partido con unos claros ideales y valores pero ustedes no están siendo ni responsables ni coherentes con su ideología les veo ciertamente desnortados y todo por su miedo a acordar con el partido nacionalista vasco con este gobierno

a los hechos y a ejecutar proyectos concretos los diferentes grupos de esta cámara mientras los objetivos se mantienen en el plano de lo difuso pues no parece que haya

pero no de los parques eólicos están a favor de la economía circular pero no de las plantas de tratamiento de residuos están a favor de los trenes pero no del que se está haciendo aquí

de hecho en cuanto se concreta la necesidad de ejecutar determinados proyectos están sin excepción en contra mientras tanto la vida sigue

representantes y aquellos y aquellas que han obtenido la confianza en la sociedad son los que asumen la responsabilidad y la incomodidad en algunos casos de tener que plantear a problemas reales

exageraciones sin sentido o las descalificaciones muy manidas como las que hemos escuchado hoy son buenos en la estrategia de criticar pero sin aportar soluciones porque claro para ello ya hay que mojarse y mojarse equivale a apostar y arriesgar y ahí

de inversión de inversión pública duplicando el presupuesto respecto al dos mil veintiuno y alcanzando una cifra récord mil seiscientos millónes de euros

su concepción su definición de austeridad inversión como motor de la economía y generador de riqueza inversión para reactivar la economía y el empleo pero también la sanidad la educación la cohesión social la igualdad la digitalización la industria o las zonas más desfavorecidas

por lo tanto presupuestos sociales inversores y como tercera clave presupuestos basados en la investigación el desarrollo y la innovación

fundamental para la competitividad de nuestras empresas desde esta constatación

en el programa de gobierno un gobierno por tanto comprometido un gobierno

y no me voy a repetir en lo que ya ha comentado la portavoz socialista con la estrategia vasca de empleo el plan

al esfuerzo que este gobierno está haciendo en materia de consolidación de plazas dotando de estabilidad y por tanto calidad también en el empleo público y para muestra un botón la oferta de empleo de cuatro mil plazas para dos mil veintiuno

a las políticas de estabilización de empleo con un compromiso firme del gobierno vasco para la reducción de la temporalidad presupuesto que dispondrá de los recursos fiscales necesarios para poder ejecutar todos sus programas y que insisto y lo digo para el señor gordillo

es gracias a nuestro autogobierno y al concierto económico porque nosotros seguiremos peleando

sino asumiendo riesgos riesgos unilaterales es curioso que usted se ponga y se manifieste a favor del concierto económico cuando hoy

y está votando en contra ciudadanos su coalición

clara incoherencia recursos que no solo a través de la vía fiscal sino que se verán completadas con los fondos europeos que llegarán

con la calidad de los proyectos presentados bien se lo merece

elkarrekin podemos izquierda unida y el partido popular ciudadanos están diciendo no a este presupuesto un presupuesto para reforzar los servicios públicos y la protección a las personas

dicen no a las nuevas oportunidades para dinamizar el empleo transformar la economía desde la sostenibilidad apoyar

sufre no es un no a este gobierno es un no a la sociedad vasca y a sus opciones de progreso y avance dicen hoy se presentan a este debate con una carpeta vacía

millónes de euros y las demás partidas son para eliminar euskera dotaciones a e i te be y a las delegaciones no es plantear una alternativa que precisamente encaje con nuestro modelo vienen criticando por ejemplo podemos la opacidad de este gobierno con los fondos europeos

nacionalista vasco para que su ejecutivo dé cuenta de los avances del plan

y eso no es lo que espera la sociedad de nosotras y nosotros y lo del pp estamos en otra liga sigan ustedes con sus cálculos partidistas leía

y a la señora muriel en la que su única propuesta es

no sé cómo lo hacemos pero siempre estamos girando girando pero ya sabe señor gordillo nosotros nos adaptamos a las necesidades de las personas y somos quienes les ofrecemos soluciones a sus problemas ustedes

no lo conseguirán mientras no ofrezca una propuesta y una alternativa real y seria a este país si fueran sensatos y sensatas palabras de la señora muriel

estarían negociando este presupuesto estarían aportando pero lamentablemente tienen un discurso que es el fiel reflejo de su posición de hoy aquí ante estos presupuestos y al que nos acostumbran en otros lares y no es precisamente lo que euskadi necesita y valora ayer leía el sesenta y cinco por ciento de la ciudadanía considera que la situación política en euskadi

en cambio solo el veintiocho por ciento considera que la situación en españa es buena o muy buena creo que les debería hacer reflexionar nuestra sociedad la sociedad vasca es una sociedad madura muy madura

ni crispación política quiere unas buenas políticas públicas que transformen la sociedad y ahí

en esta cámara para acordar para buscar lo mejor para esta sociedad para responder ante la ciudadanía y ustedes hoy se irán con las manos vacías sin nada que ofrecer más allá de sus discursos huecos propuestas ninguna descalificaciones

pese a todas las dificultades por las que estamos atravesando las cosas se hacen razonablemente bien con modelos sociales asentados y con estabilidad política e institucional quiero pensar que todos y todas deseamos lo mejor queremos el fin de la pandemia la recuperación de la economía salud trabajo y justicia social

las mismas cosas por ello ojalá cambien de rumbo con su acción política como lo ha hecho eh bildu cambiando su estrategia y trabajen por el bien común este proyecto merecía ser tomado en consideración por el resto de grupos parlamentarios por su valor

de setenta y cinco podemos pp ciudadanos y vox con lo que señor martínez zatón muy equivocados estaríamos

unos presupuestos que van en contra de la mayoría social cuando este presupuesto solo lo rechaza el veinte por ciento de los representantes de la ciudadanía

otros ejercicios den un paso adelante porque estas puertas las de

seguirán como siempre abiertas gaur gizarteari

gracias señora presidenta buenos días de nuevo a todos en plena sexta ola de contagios por covid diecinueve estamos a minutos de que sean aprobados unos presupuestos que para empezar

contemplan una notable reducción de los fondos destinados a atender las necesidades que emanan de la crisis sanitaria mientras en la calle se suceden las cancelaciones de eventos

mientras crece la intranquilidad en la ciudadanía y aún más entre empresarios sectores como la hostelería la restauración el ocio nocturno el turismo en general

situación de absoluto desgobierno se habla de cogobernanza y no tenemos ni gobernanza no hay un solo país en el que se haya apostado por regionalizar la gestión de la crisis ni uno solo un presidente desaparecido que aparece para hacer propaganda de la nada y presidentes autonómicos que se renueven en sus sillas ante la falta de liderazgo

con pataletas incluidas que animan a la desconfianza y estos presupuestos que hoy van a aprobar con la muy significativa abstención de eh bildu son más desgobierno nacional son presupuestos a la vasca más distancia con españa más diferencia más euskera más nación vasca y menos españa

necesitamos remar todos en la misma dirección recuperar el control de nuestra nación

a demandar acciones comunes a todo el territorio nacional en tiempos como los que vivimos necesitamos líderes valientes empeñados en hacer lo que se ha de hacer y no solo

la gestión de la pandemia es una prueba de ello una muestra de las sonoras limitaciones del estado de las autonomías es un fracaso en el que insisten además estos presupuestos

ni un instituto de la desmemoria ni insistir en una política

impuestas tampoco en promoción internacional de un país que no existe no necesitamos más distancia sino todo lo contrario colaboración y cooperación con nuestros vecinos

necesitamos aunar esfuerzos y concentrar las capacidades en aras de un bien común por último unos presupuestos apoyados por su nuevo socio eh bildu eso es algo que agranda además nuestra distancia infinita con estos presupuestos y saben señores del gobierno que esto es una manzana envenenada

señora berrojalbiz le digo que la culpa de que la presión sanitaria esté como está no es culpa de los ciudadanos porque no cumplan las normas de llevar bien la mascarilla le prometo que no

y no quiero terminar ya sin ese espíritu navideño que nos embarga diciendo que vox no pediría estos presupuestos a los reyes magos

muchas gracias señora presidenta bueno el debate ha sido muy interesante porque se ha convertido un poco en lo que es el gobierno haciendo oposición a la oposición en lugar

criticando lo de los demás pero bueno vamos a hacer un pequeño repaso también me han interesado mucho todas las críticas que hacía también

que ha estado casi más tiempo con el compañero parlamentario de podemos que conmigo pero bueno también me ha dedicado algunas palabras lo del retos de país y tal joe es que a mí estas expresiones retos de país acuerdos de país claro eran los pactos de estado y ahora pues dicen retos de país o acuerdos de país a mí estas patadas al castellano pero claro si ya han admitido cocretas en la real academia cualquier cosa

lo cierto es que estas expresiones ya de por sí aluden más al sentimiento que a la razón que es un poco lo que les pasa no ha mencionado usted un montón de planes y además luego entre usted y la señora berrojalbiz me han criticado en el tema de las enmiendas mil quinientos que parece

me criticaban temas como el plan de familia y cosas de estas miren ustedes su gobierno

de euskadi habían planificado ciento dieciocho millónes para dos mil veintidós y se quedaron en setenta y tres me parece alguna enmienda ha subido un pelín pero nosotros todo lo contrario planteábamos un fondo planteábamos un fondo de más de cien millónes de euros además a desarrollar

que complementara este tipo de políticas porque sí que hemos hecho enmiendas también sociales mire nuestro criterio fundamental para las enmiendas que algunas son de poco dinero otras son de mucho más ha sido sobre todo hacer un análisis de los tres últimos años de ver qué enmiendas que se repiten

no se han ejecutado o sea qué partidas no se han ejecutado o se han ejecutado poco entonces hemos dicho hombre si en los tres últimos años no han ejecutado el cincuenta por ciento vamos a reducir a la mitad la partida a mí me parecía una cosa bastante lógica pero no sé se ve que igual me he equivocado en algo ha mencionado usted la upv que por cierto tiene otro remanente de sesenta y nueve millónes de euros

pero tiene un remanente también importante se ve que el tema de la ejecución presupuestaria

es decir están todos y los grupos que apoyan al gobierno pues un poco mirando para otro lado ante la que se nos avecina

de lo que ha dicho pero lo cierto es que no es un presupuesto en absoluto que traiga que es lo que debería hacer el presupuesto traer una serie de medidas para transformar la economía transformar la administración usted se ha referido a la ley del sector público vasco creo que la ponente

es que podía ser un texto refundido perfectamente es que no aporta nada nuevo

se podía hacer un código fotocopiando la legislación vigente compendiarla y ya está no aporta absolutamente nada nuevo las cuatro o cinco cuestiones que he propuesto yo para

establecer una agencia de evaluación de las políticas públicas independiente

precisamente para esto para que estos planes que se presentan y que nunca se cumplen y que luego con un poco de suerte pasan desapercibidos porque los ciudadanos la prensa estamos a veces a otras cosas

que haya una cierta responsabilidad que se mejore para la próxima vez que se cambien

no planteaban un proyecto alternativo hombre mire hay un tema técnico cualquier enmienda al ingreso técnicamente ya es una enmienda a la totalidad porque al final lo que se establece

nosotros lo que planteábamos era aumentar efectivamente los ingresos aumentar los ingresos pero no de una vez porque eso podía afectar contablemente al dato del déficit que efectivamente usted ha dicho que se pactó la comisión mixta del concierto económico lo que planteamos es hacerlo a tres años hacerlo a tres años

un proyecto alternativo que no es el suyo ya lo ha dicho sí es un proyecto pero no es el nuestro reconoce por tanto que hay un proyecto usted se ve que no lo reconoce pero

le vamos a contar un poco nuestra visión ya verá cómo ve usted que hay un proyecto alternativo se reducen las partidas

lo que hacemos también es crear unos fondos para empresas para la formación hay que invertir en personas

también para las familias insisto un fondo que sería financiado a tres años

esa era la idea esa era fundamentalmente la idea sobre todo porque era una diferencia

no cambiaría mucho la situación respecto a tener estos presupuestos es que al final de hecho tendríamos más garantías del punto de vista del parlamento

pero lo que nosotros proponemos no son unos presupuestos de gastos son presupuestos sobre todo de inversión pero inversión real

el presupuesto tenía que venir junto con un paquete de medidas

qué debería traer pues un paquete de medidas como se ha hecho en otras comunidades autónomas que establezca una simplificación administrativa y de trabas burocráticas para las empresas que se quieran implantar

el dato el dato de la inversión extranjera en euskadi es que es malísimo es malísimo el dato que ha salido es malísimo en dos mil veintiuno recibimos menos inversión extranjera

el año anterior y no solo eso sino que probablemente sea la vez que hayamos recibido menos inversión extranjera en quince años claro hay que establecer un sistema en el que euskadi sea atractivo

lo del artículo al que se refería antes la señora berrojalbiz que escribí yo relativo al concierto económico que se titula comprender el concierto económico

para hacer de euskadi una tierra atractiva para la inversión el gobierno intenta utilizar otros mecanismos para atraer la inversión que no funciona que no funciona y qué está pasando

ese paquete de reformas tenía que traer reformas para el administrado para el ciudadano y en este caso para el empresario simplificación de la administración y simplificación interna también de la propia administración junto con un paquete de medidas de verdad que apoye al emprendedor eso es lo que tenía que haber de todas formas los presupuestos vascos vuelvo a insistir es que este presupuesto y el anterior son muy parecidos es decir

si le restamos la inflación el presupuesto es el mismo el presupuesto no sube restada la inflación el presupuesto no sube es así es que es así en el fondo a mí la lectura que hace la señora berrojalbiz de nuestras propuestas hombre evidentemente yo no estoy de acuerdo con ella creo que intento ser más respetuoso

las personas pero claro en su discurso tan ensalzador de las políticas del gobierno vasco

el tesoro personal del gobierno vasco que no quieren que nadie se le toque se han puesto yo creo que la moderna socialdemocracia usted habla de la noruega yo voy a escuchar sobre todo como modelo la sueca pero bueno la moderna socialdemocracia que se hablaba siempre que era

la de los países nórdicos pues sí que hacía referencia a esto precisamente la necesidad de invertir en el sector productivo

en las políticas sociales esa es la clave pero eso es lo que no están haciendo porque se están olvidando como siempre del sector productivo

muy difíciles y ese baño de realidad que se van a dar es una pena pero

salir de esta situación me ha parecido verla muy molesta con podemos y luego he entendido por qué porque

está apoyando al gobierno central en madrid en el que están los dos partidos que sustentan al gobierno

también a este gobierno y claro ahí se entiende el enfado que tenía la señora berrojalbiz vamos así lo ha mencionado en parte con los

luego también he visto ahí como una crítica al posible apoyo a quejas sindicales etcétera la verdad es que controlando las quejas sindicales nadie con el partido socialista eso hay que reconocérselo luego me ha hecho alguna trampilla porque claro me dice no hombre ustedes proponen reducir los sueldos de la ertzaintza

está aquí su consejero se lo puede explicar mucho mejor que yo se presupuesta siempre para ocho mil ertzainas sí claro pero es que la formación es en proporción al número de ertzainas

una partida para aumentar de verdad el gasto en formación de arkaute he sido yo pero en todo caso

por eso y con esto acabo entiendo que la alternativa que nosotros le planteemos no le encaja pero yo de verdad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

pero bueno es un spot publicitario no contrapone

usted me dice todo lo que este presupuesto incluye muy bien pero de lo que no me habla es de lo que no incluye que es lo que yo le estaba lo que yo intentaba argumentar en mi intervención por ejemplo

de lo que sí se incluye en gasto de salud que es el mayor presupuesto que ha habido en materia de salud

de cuál era nuestra propuesta alternativa en salud que creemos que era mejor y que además suponía un mayor gasto público no dice nada de la necesidad de los cuatro mil sanitarios de la necesidad de recontratar

de refuerzo por la pandemia y no dice nada tampoco de la necesidad de atender a la salud mental de que

para atender la salud mental porque lo que hay una cosa y está claro y es

persiguen una sociedad inclusiva difícilmente tendremos una sociedad inclusiva

si resulta que los servicios públicos no funcionan si resulta que hay quien no puede pagarse el psicólogo no puede pagarse el psiquiatra no puede pagarse el dentista encima tiene que esperar meses a que le atiendan en su centro de salud porque tampoco tiene la posibilidad de acudir a un médico o la medicina privada

y yo además yo he dado datos he dado datos concretos entonces claro usted me dice que no hay recortes

y no me ha respondido a estos datos concretos además que cuando hablamos de un presupuesto austero no solamente nos estamos refiriendo exactamente concretamente a los recortes de facto sino también a la ausencia

de inversión y de gasto de una década de recortes sucesivos eh bilduri zer esango nioke

habla es como si fuera la marquesa del pueblo que va repartiendo dinero sí cuando habla de los presupuestos repartiendo dinero voy a

subvencionar esta biblioteca voy a dar un poquito más una sensación de que nos ha tocado la lotería con estos presupuestos o de qué están repartiendo su propio dinero

el dinero público y gestionar el dinero público pero por su actitud de verdad que parece

algo y que nos ha tocado la lotería dice que la política de contratación del gobierno vasco es

y que siempre que surgen necesidades ahí está el gobierno vasco para suplirlas y para contratar pues

es decir me está diciendo que no existe necesidad de contratación en estos momentos de mayores

porque si el gobierno vasco siempre contrata siempre que hace falta contrata y no está contratando

que no hace falta y entonces debemos vivir en situaciones distintas

bastante feo con lo de las abstenciones usted sabe perfectamente que

explicando y sabe usted perfectamente que en una comisión la abstención equivale

la abstención simplemente está diciendo que no se entra a valorar las enmiendas de los otros grupos no se están ni apoyando ni desapoyando y lo sabe perfectamente entonces decirlo aquí de esa manera en tribunas es bastante ridículo

del amante rechazado que no puede admitir qué es que no le quieren

ofrece nada que guste nada de miedo no tiene nada que ver con el miedo eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea

bueno vuelvo a reafirmarme en la idea que me parece fundamental de que se han utilizado todas las herramientas económicas y financieras para presentar unos presupuestos con el mayor gasto público nunca antes planteado

de euskadi la recuperación del empleo y la transformación el rigor y la responsabilidad en la gestión de las cuentas públicas ha sido siempre una impronta de los socialistas vascos que también hemos querido dejar patente en estos presupuestos cumpliendo

pero también aprovechando la flexibilidad que otorga la comisión europea al suspender de forma excepcional las reglas fiscales lo cual agradecemos y nos alegramos infinitamente de estas políticas

y lo principal hoy aquí es que no se han presentado enmiendas parciales que cambiaran el modelo

en ningún ámbito elkarrekin podemos izquierda unida ha rechazado una oferta de negociación con compromisos en salud en educación en medio ambiente vivienda y empleo lo que podría haber mejorado un presupuesto perfectamente alineado y en la misma sintonía y líneas de actuación con las de otros lugares donde su grupo tiene responsabilidades de gobierno la mejor política de inclusión y de cohesión social es precisamente reforzar y mejorar todas estas medidas no podemos pasar este ámbito sin lamentar la ruptura de la negociación que proponía incrementar en treinta millónes

para la implantación de la estrategia de atención primaria y realizar cambios organizativos o los once coma cuatro millónes

de los colectivos y personas en riesgo de exclusión o incrementar en cinco millónes la compra de vivienda pública para el parque de alquiler social y hablan de educación y de segregación escolar pero en la oferta de negociación también se incluía un incremento de ocho millónes del plan de inversiones para cubrir los patios de centros públicos

como activar oficinas de escolarización municipales en colaboración con los ayuntamientos impulsar los consejos escolares municipales o mesas locales

por medio de estrategia contrato programa realizar un diagnóstico para estudiar el rol de diversos factores de oferta y demanda que se consideran condicionantes de la segregación escolar

entre otras medidas estos son recortes no no son recortes esto es la forma que tienen de justificar su exclusión pero su ruptura en la negociación abría una oportunidad a otro grupo parlamentario

que ha concluido con un acuerdo presupuestario que ha puesto en valor la utilidad del ejercicio de la política del acuerdo y del diálogo lo que sin duda redundará en beneficio de la sociedad vasca y en cuanto al grupo vasco popular ciudadanos

el presupuesto sube un siete coma seis por ciento a ochocientos ochenta y ocho millónes de euros real previsto para el dos mil veintidós es de seis coma siete por ciento

han presentado sus enmiendas parciales que tampoco representan ningún modelo alternativo después de justificar básicamente su rechazo al proyecto de presupuestos por la

y saben que euskadi es una de las comunidades autónomas con mayor ejecución presupuestaria de españa

en plena pandemia noventa y seis coma tres por ciento en obligaciones reconocidas y con datos a mes de noviembre de casi el ochenta y nueve por ciento del presupuesto ejecutado en todas las empresas públicas privadas administraciones se trabajan con previsiones y se trabaja con ejercicio real y hay desviaciones

y en lo referente a las previsiones sabemos que existen muchos factores que hacen variar los indicadores económicos de todos los órganos estadísticos tanto a nivel internacional europeo como del propio gobierno vasco precisamente por ello hay un equipo técnico analizando la situación para poder hacer propuestas de adecuación

no es tan negativo contar siempre con un remanente al menos un poco de remanente y más hoy en día teniendo en cuenta

coste de la deuda rentabilidad del mercado muchas gracias eskerrik asko

eta uste dugu zentzu horretan pues que ese refuerzo que se plantea de treinta millónes en la atención primaria para reforzar el personal administrativo médico y de enfermería el compromiso para afrontar

del alquiler que sea propio ajustado a nuestras especificidades y el impulso de

creo que nada desdeñable destinada a la atención a personas sin hogar una subida que revierte los recortes a las ayudas de emergencia social para hacer frente al atraco de las enérgicas

y las comunidades energéticas supone una mejora importante a la respuesta que estos presupuestos que sí o sí van a salir adelante y van a plantear sin las mismas eta denbora agortzen zait eta

que se tome para poner freno a la extensión del virus tiene que venir acompañada de medidas de apoyo

estén bien diseñadas y ofrezcan garantías dinero en estos presupuestos hay para eso

si la abstención es no entrar a valorar el contenido de las enmiendas

desapóyenos a nosotros le pido desapóyenos a nosotros

poder abstenerse con su voto no creen ustedes que son valientes dónde ve usted señora gorrotxategi el recorte es el mayor presupuesto de la historia ya está

el mayor de la historia y no solo en cuantía ya se lo he dicho en mi primera intervención también en su orientación a la inversión a la cohesión social a la educación y a la salud dígame usted si podemos ha podido

mejorar o hacer unos presupuestos más expansivos ambiciosos e inversores que estos que hoy estamos aprobando aun así aunque usted no quiera y no me quiera igual será porque soy una marquesa y eso es muy burgués yo siempre tendré un sitio y un hueco en mi agenda para citas con usted para hablar

para estos presupuestos porque yo creo que estarán de acuerdo conmigo

esta crisis es por lo que entiendo no cuestionan de fondo este presupuesto y solo plantean más gasto para aquello que el gobierno vasco

si fuera necesario aumentar ciertas partidas aumentar ayudas a sectores afectados por la pandemia la salud la educación

actual pero eso no significa que sea inamovible y eso sí sin que este mayor gasto

afecte a la solvencia de las cuentas públicas porque la solvencia está garantizada un déficit del dos coma dos por ciento y la deuda del dieciséis coma nueve por ciento ingresos públicos eficaces la reforma fiscal del dos mil dieciocho se ha demostrado eficaz porque a pesar de la pandemia se están logrando los objetivos una positiva evolución de los ingresos incremento del catorce por ciento a noviembre

unida a una recuperación de la inversión la actividad y el empleo se va a disponer de fondos europeos para apoyar proyectos estratégicos de inversión y transformación

corredor vasco del hidrógeno los servicios públicos esenciales están garantizados salud educación y protección social se ha incrementado un cincuenta por ciento de los recursos destinados a inversión pública y un doce

ambiciosos de consolidación social y de nuevo impulso económico y sí le confieso

de la marmota porque por más que el consejero azpiazu le explique cada dos semanas el origen de los remanentes fruto de la meditada emisión de deuda y no de la inejecución y de los niveles de ejecución que sus enmiendas por cierto se basan en ejecuciones no a diciembre sino a septiembre octubre usted repite repite y repite lo mismo no semana tras semana lo mismo con las previsiones

no sé cómo podemos explicarlo mejor un excel una pizarra no sé o como usted quiera nosotros somos muy modernos

pero veo que no es el método sino su voluntad y facultad de interiorizar esta realidad de querer mantener su relato porque este gobierno se adapta como ve se actualiza y es lo más realista posible frente no sé si le

agorero en sus mensajes le decía nos encontramos en un punto de inflexión y contamos con una base sólida y acordada

plan de ciencia tecnología e innovación dos mil treinta estrategia de internacionalización

basque green deal programa de transición energética y economía circular plan de digitalización y basque cuatro punto cero euskadi next para los fondos europeos un gobierno

necesidades derivadas de la pandemia sigue manteniendo una estrategia orientada a convertir los retos en oportunidades eta

indarguneak indarguneak ere baditugu eta horiei ere balioa ematen jarraitu behar diegu la madurez y responsabilidad de la sociedad vasca

de la juventud la capacidad de adaptación y la participación de las y los trabajadores el diálogo social y la colaboración público privada contamos con una cultura de colaboración público privada

humano sostenible que se ha demostrado eficaz con una estrategia acordada en berpiztu la agenda dos mil treinta

con la prioridad de la inversión la innovación y la industria contamos con el concierto económico y la capacidad de nuestro autogobierno mayor fortaleza

estos son los mimbres de un país y de un gobierno en marcha eta daukagun erronka handia da krisialdi hau euskadi eraldatzeko baliatuz horren bidez etorkizuneko lehiakortasuna